hablemos de sueños y hablemos de dispendio de dinero público con cargo al conjunto de los ciudadanos vascos y qué se puede hacer

y tratar en última instancia de localizar a los responsables políticos a los responsables políticos de este dispendio de este derroche

y conseguimos que la consejera nos responda y diga qué es lo que el gobierno piensa hacer a partir de ahora el sueño automovilístico del partido nacionalista vasco tenía tres patas y digo el sueño y digo el sueño automovilístico y digo el sueño automovilístico

epsilon proyecto empresarial sustentado prácticamente de forma exclusiva en las ayudas públicas aportadas mayoritariamente por el gobierno vasco

un fiasco y el dispendio de cuarenta millónes de euros de dinero público en nuestra opinión debemos localizar a los responsables

hemos pedido la creación de una comisión de investigación en este parlamento cuente con el apoyo no sé si de todos los grupos pero al menos de una mayoría de grupos de una mayoría de parlamentos que tenga como objetivo la

de este fiasco arakamendi una ciudad del motor que los nacionalistas querían construir en la llanada alavesa esta segunda pata

quedó en nada e hiriko según usted señora consejera una idea novedosa con capacidad de cambiar el paradigma

hiriko lo promovieron dos colectivos la asociación para el fomento de actividades industriales y deportivas de automoción

y un supuesto centro de innovación localizado en bermeo

denokinn veamos presidente de afypaida el señor jesús echave

del partido nacionalista vasco en el anterior consejo de administración de kutxabank secretario de la asociación el señor iñigo antia

en vitoria estrecho colaborador del anterior presidente del partido nacionalista vasco en álava señor iñaki gerenabarrena y hasta agosto del mil doce consejero de la sociedad que se encarga

del pnv qué cosas señora consejera pasan en euskadi uno de los responsables de denokinn señor

del gobierno vasco hiriko ha absorbido millónes de euros de dinero público gran parte de los cuales

a cambio de apoyar unos presupuestos que públicamente consideró como muy negativos el partido nacionalista vasco en el congreso recuerdo perfectamente dijo que el presupuesto presentado por el gobierno socialista era muy negativo para los intereses de los ciudadanos

de unas elevadas cantidades de dinero a destinar a este proyecto que hoy es un fiasco ciertamente curioso señora consejera lo que ustedes consideraban una idea novedosa con capacidad de cambiar el paradigma de movilidad urbana está hoy en vía muerta ese coche

y mientras tanto personas afines al partido nacionalista vasco se han aprovechado del botín de esas cantidades de dinero público destinadas por diferentes instituciones y aportadas por los ciudadanos vascos resulta que de esas cantidades de dinero público

del partido nacionalista vasco hay datos interesantes el señor echave

por alquilar a hiriko unas dependencias de su propiedad la firma gastó en sueldos en dos mil diez

curiosamente en dos mil diez la firma solo tenía en nómina a antia si

que alguna cifra o alguna cuestión no sea exacta pero parece ser que de momento sí

pero de los mismos propietarios y a esto añadimos el paradero desconocido de uno coma dos millónes de euros entregado a brw otra firma de los integrantes

el ex director de mercedes armando gaspar ha percibido la friolera de cuatrocientos cuarenta y uno

y un anticipo previo lo que da como resultad una nómina mensual

a los ciudadanos vascos les ha ido muy mal a una serie de personas les ha ido muy bien a echave no le ha ido mal una de sus empresas

por alquilarle una serie de oficinas los trabajadores denuncian impagos y denuncian una gestión irregular en fin estamos hablando de millónes de euros que parece ser dilapidados se nos vendió un proyecto que generaría empleo que sería positivo para el conjunto de la sociedad vasca y lo que tenemos es un enorme

involucradas con personas del partido nacionalista vasco como responsables políticos en nuestra opinión de una serie de decisiones

del dispendio de dinero público la pregunta que le hacemos es si

adoptar cuantas medidas sean necesarias para recuperar las ayudas públicas aunque desde luego habría mucho que realizar habría que echar la vista atrás y habría que investigar a fondo este asunto

a los responsables políticos de lo que ha ocurrido aquí es un hecho ciertamente grave esto hay que investigarlo en todo caso escuchamos sus explicaciones gracias

yo entiendo que usted es parlamentario único y entiendo que no puede llegar a todas las comisiones

de esto hablamos en una comisión que tuvimos

en reiterar las explicaciones en lo que responde sobre todo a las ayudas al proyecto hiriko subvenciones a un proyecto de investigación que se dieron desde el programa etorgai del departamento en aquel momento de

usted me ha mezclado un poco las cosas entiendo que la retórica

me mezcla mi posición de consejera con mi posición de miembro del partido

como consejera de este gobierno en lo que responde a ese proyecto

ha tratado de mezclarlo con epsilon y arakamendi vamos a responder a lo que vamos a responder

en comisión de que el proyecto hiriko se presentó desde los inicios como una idea novedosa

y era una idea que no era original nuestra que era una idea

a la situación en la que se adquirió en cuanto

no me voy a referir a las del congreso de los diputados a pesar de que siendo yo parlamentaria en el año dos mil doce recién llegada una de las primeras en la primera comisión de hecho del departamento de industria en aquel momento el señor caldera presentó a favor de la implantación de este tipo de tecnología y de este vehículo en todo el estado español luego una cosa es

dónde nos encontramos en este momento y tampoco me gustaría confundir dos cosas que usted también ha tratado de confundir que es la gestión empresarial que se debe a su consejo de administración y entiendo que allí tendrán que darse cuenta de esos

elevados a su juicio y que quizá podamos compartir pero esos son en referencia a consejos de administración de personas privadas eso es otra cosa no es la que nos ocupa hoy

en referencia a un proyecto de investigación muy concreto los proyectos de investigación

el concreto en este caso conoce usted muy bien que son programas de investigación en concurrencia competitiva a la que acuden

en colaboración que se evalúan de acuerdo a unos criterios que son públicos evidentemente en la convocatoria correspondiente y que son evaluados además por unos evaluadores externos este proyecto como no puede ser de otra manera se evaluó también por esos evaluadores externos y consta toda esa documentación si hacemos referencia a en qué año

se comienza a evaluar se presenta en la convocatoria de dos mil diez en primer lugar y en conjunto se presenta una solicitud de ayuda de subvención a la investigación insisto

los evaluadores analizan el proyecto lo ven interesante tengo toda la documentación pero la voy a resumir lo ven interesante sin embargo sí dicen que hay unos ciertos costes de personal de investigador que están inflados con lo cual

concesión de ayuda a investigadores a lo que suele ser en el programa general y que además quieren no dar subvención a un proyecto trianual como se ha presentado si no que se va a hacer un proyecto anual y evaluar el resultado y en función de eso continuar se acepta una subvención de un millón novecientos sesenta y tres mil seiscientos treinta y uno euros y

consigue o se evalúa el proyecto y se observa que no se han cumplido todos los objetivos iniciales por tanto en lugar de

por tanto se cumple en unos términos en los que está además la evaluación realizada como se hace siempre y se

el año siguiente se vuelve a presentar el proyecto en este caso ya mucho más ambicioso

subvencionado vuelve a realizarse la evaluación y si bien en este caso la evaluación dice que el proyecto ha madurado mucho y que es mucho más consistente y está mucho mejor planteado se acepta aproximadamente algo menos de la mitad

y de nuevo tras la evaluación de los objetivos conseguidos por el conjunto de los participantes que por cierto son unos cuantos unos cuantos participantes todos ellos empresas locales empresas de euskadi

vuelve a presentarse la continuación del proyecto en este caso ya reconducido y reelaborado y se presenta un presupuesto de cuatro millónes trescientos diecinueve mil quinientos treinta y tres euros

y la subvención final es de novecientos veintisiete mil euros sí estamos observando que el proyecto va cumpliendo una serie de hitos pero que no finalizan todos los objetivos ambiciosos que se pretenden llevar a cabo no obstante insisto de lo que se presenta a lo que se acepta

lo que se subvenciona se observa que hay un seguimiento del proyecto de investigación bastante exhaustivo en total la subvención en las tres convocatorias a las que acude

desde ese punto de vista sí señalar que lo que ha sido el seguimiento de este proyecto de investigación

como en la consecución de objetivos y la subvención correspondiente ha sido absolutamente transparente y como se ha realizado en cualquier otro proyecto de la convocatoria etorgai

otra cosa es que evidentemente de los objetivos que se plantean inicialmente a dónde nos encontramos en este momento no se han conseguido los objetivos y en eso estamos de acuerdo pero sí me gustaría que hiciéramos esa diferencia y sobre todo cuando habla usted de un tema que es

que se han beneficiado de este proyecto las ayudas que se han dado son a unos determinados hitos de investigación que como usted conoce aparecen en todos los proyectos

repito de lo presentado a lo aceptado y a lo subvencionado va un trecho bastante importante y se observa que el seguimiento ha sido importante por tanto desde el punto de vista

exhaustivo y ha sido llevado a cabo como no debe ser de otra manera como se hace en cualquier proyecto de investigación y desde luego no nos cabe ninguna duda de que se ha realizado correctamente

señora consejera sabemos perfectamente que usted compareció en la comisión correspondiente de este parlamento y dio sus explicaciones nosotros hemos leído las explicaciones dadas por usted y a pesar de eso pensamos que hay sombras detrás de este proyecto y hay

detrás de las subvenciones de dinero público que se ha concedido principalmente porque ha sido y ha resultado un fiasco y un verdadero fracaso por lo tanto hay una serie de responsables políticos que han tomado una serie de decisiones que han sido evidentemente erróneas han llegado a perjudicar al conjunto de la sociedad mientras que determinadas personas afines al partido nacionalista vasco han salido beneficiarias parece evidente si observamos aunque sea únicamente por encima los sueldos que se han venido pagando y en fin determinados arrendamientos que se han producido

trasvase de beneficios entre unas empresas y otras empresas afines parece evidente que algo raro hay detrás de este proyecto y por lo tanto nuestra obligación

vasco que eche la vista atrás en este asunto y trate de despejar si puede

a impulsar las medidas necesarias para saber qué es lo que ha pasado ahí

nosotros nuevamente como hemos hecho en el caso de epsilon pediremos el apoyo al resto de grupos para que en este parlamento se cree una comisión de investigación

asuntos que han ocurrido en euskadi en la más absoluta penumbra queremos saber la verdad usted dice que es consejera del gobierno vasco y ciertamente yo no le he señalado a usted como miembro del partido nacionalista vasco y enseguida ha venido a decir algo así como que usted

no importa que usted sea una recién llegada y que lleve apenas un año en el cargo de consejero del gobierno vasco creo que es responsabilidad del gobierno

un relato de los hechos ocurridos y he pedido también a usted que trate de aportar más luz sobre la materia y seguimos

le he señalado una serie de datos usted me ha hecho un relato pormenorizado e incluso

ha cumplido una serie de hitos de investigación y que ha habido un seguimiento exhaustivo del proyecto de investigación pero cuál ha sido el resultado definitivo de este proyecto millones de euros de dispendio de dinero público este es el resultado

haber una serie de responsables políticos que actuaron mal y por lo tanto esto es lo que nosotros queremos vislumbrar y queremos señalar localizar a los responsables políticos de esto que consideramos que es una especie de corrupción no sé si legal o no pero en todo caso una corrupción evidente porque la mala gestión o el dispendio y el derroche de dinero público en nuestra opinión

y por lo tanto tenemos que localizar a esa serie de personas que han venido actuando de esta forma usted insiste en que todo se hizo bien

erróneas a al menos hubo errores evidentes insisto porque el resultado ha sido el que es y por qué el partido nacionalista vasco

puso tanto empeño en apoyar un proyecto de presupuestos socialista que consideraba que era negativo para el conjunto de la sociedad ha cambio de dinero para este proyecto detrás del cual había personas afines al partido nacionalista vasco ya sabemos que el partido nacionalista vasco ha negociado de la forma en que ha negociado con los diferentes gobiernos de españa pero es ciertamente curioso que

público para este proyecto un proyecto fracasado y detrás del cual había responsables del partido nacionalista vasco personas

cuando menos por lo tanto y responsabilidad política y derroche de dinero público seguramente también corrupción nosotros pensamos que es necesario impulsar

a este asunto para saber qué es lo que ha ocurrido gracias eskerrik asko maneiro jauna erantzuteko

señor maneiro precisamente no he querido escudarme en mi

por este gobierno vasco por tanto he pretendido hacer un análisis bastante pormenorizado de cómo ha sido y una cosa son como usted bien sabe los proyectos de investigación precisamente son subvenciones por instituciones públicas

que en ocasiones como también todos los presentes en esta cámara sabemos no conducen a ningún sitio pero simplemente hacen avanzar la ciencia y a partir de ahí se genera conocimiento

son una ayuda a la investigación y eso es lo que pretenden

por ejemplo en lo que hace referencia a las partidas económicas a tarifas horarias de los investigadores y se reducen a las tarifas habituales

le voy a leer textualmente por último en el ámbito de la mano de obra en uno de los años en el año dos mil once concretamente

no voy a hacer referencia a los actores que superan con creces los cincuenta euros de tarifa horaria

por tanto sí se ha hecho un seguimiento del proyecto de cómo se ha presentado

pero sí me gustaría dar un paso más y decir que no es del todo cierto que no se ha conseguido lo que se quería y le voy a leer precisamente un informe elaborado por

por cierto como servicio técnico acreditado por el ministerio de industria

donde dice en la configuración actual el vehículo puede ser técnicamente validado y homologado de forma inmediata para ser vendido tanto en estados unidos como en japón bueno habla de unos costes determinados y

no es baladí hasta donde hemos llegado dice que en este momento también

que para una categoría de vehículo superior como un turismo

básicamente aquellos relacionados con la seguridad y otros se convierten en mucho más exigentes y sería previsible la necesidad de una readaptación del proyecto desde su estado actual

también afirma que por nuestra experiencia los usuarios finales de este tipo de vehículos por ejemplo

no tienen exigencias específicas sobre otro tipo de aspectos como los que decíamos en un vehículo turismo y por tanto dichas categorías podrían ser utilizadas o este vehículo podría ser utilizado dentro de dichas categorías de forma inmediata bueno y continúa

por tanto desde el punto de vista de investigación se ha hecho el seguimiento adecuado y no solo eso sino que se ha acudido a una empresa homologadora certificada por el ministerio de industria y se ha llegado a esta conclusión como decía en mi intervención en la comisión correspondiente el proyecto está en fase de pre homologación y es el momento de que los privados asuman

comercialización e industrialización pero el objetivo de investigación del proyecto ha dado sus frutos y está además acreditado por una empresa que no es cualquiera sino que es una

señora consejera las directrices de ordenación del territorio aprobados en el año

autónoma el diez de enero de dos mil diez la consejera de medio ambiente firmó una orden por la que aprobaba inicialmente el plan territorial forestal de la comunidad autónoma dado que a día de hoy

cuestiones en qué fase de tramitación se ha encontrado usted a la

sí es cierto que esas directrices de ordenación territorial se aprueban en el año noventa y siete

por hacer referencia usted hablaba del dos mil diez se inicia la redacción del documento en el dos mil uno

cinco años después en noviembre se produce la aprobación provisional y en octubre de dos mil doce existe un informe favorable de la y se prepara el pts para su aprobación definitiva por el consejo de gobierno así me lo he encontrado yo esto es

cuando he llegado no voy a entrar a valorar toda la

pero en el transcurso de este proceso además se ha producido la aprobación de la ley diecisiete barra dos mil ocho de política agraria y alimentaria que

que regula aspectos relativos a suelo agrario y que deben ser tomados en consideración a la hora de articular los instrumentos básicos

agroforestal como marco en el que se debe considerar además durante la tramitación tan larga de este pts se ha realizado una evaluación ambiental

vigente y todo esto llevó a que en marzo de dos mil doce el informe definitivo de la viceconsejera de medioambiente fuera positivo

administrativas correspondientes así como en la normativa agraria y de suelo requerido en este momento por tanto la

de política agraria y alimentaria del país vasco en la fecha de veinticuatro de octubre acordó por unaminidad proceder a la revisión de este plan

con el compromiso de no modificar la parte vinculante de la matriz de usos del mismo

opere como marco de referencia para la ordenación del espacio rural vasco dar respuesta a la regulación del suelo agrario que establece la ley diecisiete barra dos mil ocho de política agraria y alimentaria

a los planes territoriales sectoriales dotar a las administraciones agrarias de la referencialidad adecuada en la aplicación

adaptar su contenido al ámbito de determinación que corresponde

y dotarlo de un mayor grado de coherencia tanto interna como respecto a la normativa y a la realidad del sector por tanto tras este acuerdo unánime nos encontramos trabajando para valorar

desde la perspectiva sectorial cruzarlos con sensibilidades distintas y competencias de distintos ámbitos como son las diputaciones forales que no hay que olvidar que tienen muchas competencias y

señora consejera hace pocos días nos decía un portavoz de su grupo del grupo nacionalistas vascos que hacer un pts salía muy caro

con los tiempos y modos que ustedes utilizan dos mil uno dos mil trece finales del dos mil trece como decía usted señora consejera el pts agroforestal tiene como objetivo principal proteger el suelo el suelo dedicado a la actividad agrícola ganadera y forestal definir los suelos de alto valor estratégico además de clasificar de manera más concreta los distintos usos del suelo estamos hablando

y fundamental para el desarrollo de las actividades agrarias agrícolas ganaderas y forestales y debemos establecer las medidas

que hagan que conviva de manera pacífica con el desarrollo de nuestras ciudades nuestro pueblos de la industria de las

como se establecen cuales son los puntos donde se

ustedes dejaron el gobierno en el dos mil nueve sin conseguir una aprobación de este plan

dispuesto para llevar al consejo de gobierno para aprobar y de repente surgen todas las dudas todas las dudas que ustedes

porque usted dice modificaciones que voy a incorporar pero es que luego vienen las modificaciones de las directrices de ordenación del territorio claro vamos a esperar a que también se aprueben esas modificaciones así no se aprueba el pts de agroforestal en la vida porque siempre va a tener usted elementos

entonces señora consejera usted tiene que tomar una decisión pero ya lo que no podemos estar es pendiente de lo que vayamos a incorporar hay una parte que debe ser fija y otra parte que debe ser dinámica

la vamos modificando claro que sí pero vamos a aprobarlo de una vez no puede ser que llevemos trece años doce años en esta situación porque como usted mismo ha dicho y yo se lo digo hay cosas que hay que definirlas hay que marcarlas hay que proteger algunos suelos estratégicos

cómo convivimos con el avance de los demás sectores de las infraestructuras de los

señora consejera me gustaría tener un compromiso mucho más contundente por su parte si no van a modificar la matriz sino

y vamos a fijar las partes dinámicas que efectivamente se van a tener que ir modificando pero

entonces no podemos estar permanentemente pendientes de aquello que hay que incorporar para justificar la no aprobación aquí hay que tomar una decisión
y espero que sea rápida y pronto eskerrik asko lópez de ocariz anderea

pero sí quiero decirle una cosa que precisamente en esa reunión de veinticuatro de octubre si esta postura que hemos traído hoy se caracteriza por algo es por un consenso no una unanimidad de todas las instituciones presentes en esa comisión en dos sentidos

no modificamos esa matriz y vamos a modificar solo unas ciertas partes lo más rápidamente posible pero no podemos dejar pasar esta oportunidad para mejorar el texto y deshacer los desajustes que existen como consecuencia de que ha sido un proceso tan largo por tanto hay una serie de cosas que como consecuencia de cambios sociales y legislativos hay que introducir hoy no voy a esperar a los de pasado mañana pero los que hoy existen es evidente que hay que introducirlos

el tema porque se ha tratado anteriormente y para no repetir lo que se dijo tampoco en la comisión creo que sería más importante

compartimos con el anterior proponente que epsilon e hiriko comparte varias cosas en común comparten por ejemplo que son proyectos altamente subvencionados

administraciones públicas son proyectos que ocupan a personas muy concretas en este caso muy bien relacionadas también con el poder político y eso es lo que nos preocupa nos preocupa también que desde

que los altos sueldos que puedan haber cobrado o cobraron en su momento sea el consejo de administración quien los dicte y luego también dos consejeros

refiriéndose a la estructura de costes de las empresas de euskal herria si no se puede hablar de los sueldos yo creo que de los costes salariales más bien nos vendría

de los y las trabajadoras por otra parte nos preocupa también como euskal herria bildu y era sobre todo a colación de la pregunta que le realizábamos

como afectado dentro de los procesos que se están abriendo contra las personas que

dinamitaron el proyecto hiriko existe algún tipo de voluntad política por este gobierno de recuperar el dinero público invertido

barato que sale muy barato para proyectos muy mediáticos pero en absoluto rentables mientras que los proyectos rentables de este país van cayendo el sistema productivo se nos escapa por las manos

las cláusulas que se exigen para dar esas subvenciones o concesiones nos tememos que son directamente puestas para que

y nos ha asustado algo que hemos escuchado aquí que el proyecto hiriko finalmente podría llegar a ser rentable le pregunté en comisión y me vuelve a preocupar

de hiriko me está usted hablando de eso sinceramente me preocupa y me preocupa que sirva para

de las personas gestoras de hiriko y hacer de este caso de corrupción no sé si legal pero sí estructural posiblemente por las relaciones que existen entre el poder político y las empresas y sobre todo como se conceden determinadas subvenciones y a que proyectos

que otros tantos millónes formen a pasar parte del patrimonio privado de una serie de gestores y no sean recuperados por la administración pública vasca

le agradezco señor lópez de munain que tratemos de avanzar en este tema porque si no parece que estamos dando vueltas siempre alrededor de lo mismo casi empezando contestándole

en personarnos cuando hablaba y le hacía referencia al señor maneiro de la existencia de este informe de homologación hacia únicamente referencia a que si existe una inversión

producto sea por alguna de las empresas que existen en ese momento o sea por alguien de fuera que quiere invertir en la comercialización del proyecto este proyecto podría ser viable

y con modificaciones adicionales que llevarían más tiempo en otros casos eso es lo único que he pretendido decir y sí me gustaría dejarlo muy claro en ningún caso hablamos ni de la venta de alguna forma de esa licencia que se adquirió evidentemente y que esa licencia además adquirió con un dinero público no podemos dejar pasar esa oportunidad en eso estaremos los primeros de la fila y permítaseme la expresión coloquial en considerar eso como

con ayuda a investigación del gobierno vasco en este caso tampoco vamos a permitir que sea vendido a un tercero eso que no le quepa a usted la menor duda

sí quiero insistir en algo que estaba diciendo y hablábamos también en comisión de los proyectos que son altamente subvencionados pero es que este tipo de proyectos a los que estamos haciendo referencia son en todo caso y no tiene usted más que mirar las convocatorias

subvencionados porque son proyectos de riesgo todavía son proyectos que tienen un índice muy importante de investigación y en la parte de investigación en la mayoría de los casos nos gusta llegar a conclusiones y a nuestras empresas les gusta llegar a un producto pero no siempre no en el cien por ciento en de los casos se consigue

pero no siempre por las características insisto que tiene este proyecto y todavía estamos además en una convocatoria que es etorgai es decir todavía estamos

y es ahí donde decíamos que los resultados de investigación son aceptables los resultados de investigación han llegado a donde tenían que llegar o donde se preveía que retenían que llegar y a partir de ahí todavía les queda un recorrido y desde luego permítame la expresión pero no le voy a tolerar es que la forma en la que se dan las subvenciones está perfectamente contrastada pero no hoy ni hace cinco años ni hace diez es una convocatoria contrastada valorada por agentes externos y desde luego donde nunca hemos tenido un problema

se trata de una convocatoria que después está auditada por la unión europea nunca hemos tenido un problema por tanto si usted conoce algún problema sí me gustaría analizarlo con usted pero

y sufre auditorias múltiples la última la de la unión europea eskerrik asko eskerrik asko

cuando usted nos habla de los proyectos altamente subvencionables lo que yo no entiendo es cómo se puede hacer un proyecto altamente subvencionable en el que el riesgo total recae sobre la administración pública

la rentabilidad del mismo más allá del cambio del paradigma

eso sí que me sigue preocupando y por otro lado me da miedo ese conformismo a la hora de hablar de que muchos proyectos salen pero con los que no salen qué pasa con esas subvenciones públicas

se está estudiando alguna forma de revertir ese dinero público invertido y recuperar esa inversión

se va a personar el gobierno vasco como afectado en caso de que haya habido mala praxis eso es lo que nos gustaría saber eskerrik asko

y empiezo por el final otra vez si se produce una mala praxis y se demuestra evidentemente nos personaremos pero no se ha producido en este caso

brevemente decirle que la investigación tiene muchos ciclos uno es la investigación básica donde todo es subvención y no hay resultado alguno usted cree que estamos dilapidando el dinero en ese caso

de ese conocimiento tratando de trasladar la empresa y tratando de conseguir un prototipo que es este caso y tampoco estamos dilapidando el dinero y a partir de ahí estamos en el desarrollo del producto la investigación tiene muchos ciclos y hay una parte que es muy subvencionada y otra que es incluso

se ha actuado como si de su cortijo se tratara despreciando

por la vía de los hechos al margen de cualquier procedimiento haciendo de este modo imposible e

según los representantes de las trabajadores y trabajadores la propuesta

el despido de más de doscientos trabajadores y trabajadoras necesarias para la gestión de la renta de garantía de ingresos quién va a gestionar la rgi

consolida un número insuficiente de puestos de trabajo para ofrecer un servicio de calidad por lo tanto se continuará con servicios privatizados

supone una bajada salarial para la mayoría de la plantilla por otra parte consolidan puestos que se han dado a arbitrariamente

de una gran parte de la plantilla que se haría sin tomar en consideración

movilidad forzosa de muchos trabajadores y trabajadoras

a criterios y análisis que no han sido acordados astakeri horren aurrean lanbideko langileak mobilizazioak burutzen ari dira aurkeztu zaien

lakua propone reducir la plantilla de lanbide en previsión de que baje el paro ez dugu ulertzen ez da egia eta gainera

por área de trabajo las actuaciones de mejora llevadas a cabo a nuestro juicio son las siguientes

entre las más importantes han sido la identificación de acciones específicas para oficinas con mayor demora la revisión de los protocolos

la actualización de documentos que facilitan el acceso a la tramitación un plan de colaboración externa alianzas con diferentes administraciones y entidades que acompañan en el proceso de configuración y tramitación de las ayudas y el desarrollo de un proceso de control de calidad en la atención a los usuarios

las actuaciones más relevantes han sido simplificar la tramitación mediante la reducción del número de documentos requeridos en cada expediente

entre las diversas administraciones públicas que tienen algo que ver con cada uno de los expedientes externalizar el escaneo de expedientes que posibilita a los profesionales dedicarse a tareas de tramitación aprovechamiento óptimo del plan de choque por las oficinas con el objetivo de reducir la demora

y que tal y como señalé en mi comparecencia de presupuestos finalizará este año y que es un plan que venía de la época anterior

realizar un diagnóstico sobre procedimientos por oficina para la optimización de todos los recursos humanos

ante posibles incumplimientos revisión suspensión extinción establecer un plan de control de calidad de las diferentes resoluciones la revisión de los procedimientos de tramitación para asegurar la claridad y el entendimiento de las comunicaciones por parte de los ciudadanos

establecidos en la normativa en el área de verificación y control hemos implementado los medios informáticos necesarios

hemos desarrollado vías de colaboración institucional de un modo formalizado con aquellas instancias administrativas consideradas prioritarias

para la mejora de la atención de colectivos específicos que así lo requieran con respecto a las notificaciones las acciones correctoras han sido el establecimiento de un procedimiento común

para el tratamiento de la información de las personas físicas y la gestión de sus cambios habilitar el procedimiento de notificación en mano que ahorra tiempo en el procedimiento

modificaciones el aplicativo para la correcta gestión de las incidencias en las notificaciones

en el área de pago y gestión económica se ha dispuesto de un procedimiento de pago por incidencias que permite reparar errores en el pago sin esperar

en el apartado dedicado a la vinculación con la activación las actuaciones de mejora que hemos desarrollado han sido el establecimiento de planes específicos de reinserción

que no tienen la condición por lo tanto de demandantes de empleo así como el fomento de la participación en servicios para la reinserción laboral de las personas beneficiarias de una empleabilidad muy baja desarrollar también un modelo de seguimiento de la participación de beneficiarios de rgi

que se gestionan desde lanbide y finalmente se han dispuesto procedimientos comunes a las direcciones para la derivación de usuarios

y la activación laboral usted misma reconocía en su intervención

aunque para usted era bien poco le voy a dar algunos datos el resultado de todo esto

es que mientras en enero de este año únicamente el cuarenta y nueve por ciento de los expedientes de renta de garantía de ingresos y de prestación complementaria tramitados en lanbide se hacían dentro del plazo legal establecido de dos meses a fecha de hoy estamos en el setenta por ciento esa es la mejora

no es nada autocomplaciente a mí me siguen preocupando y mucho el otro treinta por ciento ese es el objetivo de nuestra actuación el treinta por ciento

de tramitar en el tiempo legalmente establecido y en ello nos vamos a empeñar pero si nos remitimos a los que dentro del conjunto de expedientes se consideran prioritarios porque su tramitación y resolución implica el acceso de personas que lo necesitan a los recursos previstos por la ley

se elevaría hasta el setenta y cinco por ciento y si de entre todos ellos tenemos en cuenta los que finalmente resultan favorables es decir los que van a

al setenta y siete por ciento insisto el margen de mejora es importante tenemos la obligación no solo moral sino porque enfrente tenemos un derecho subjetivo al que dar cauce

perciban esa renta de dignidad en el tiempo que la ley marca como máximo es decir en el tiempo de dos meses insisto la mejora es evidente pero hay mucho camino por recorrer y a pesar de ello seguiremos con el proceso de mejora mediante

que creemos relevantes que creemos importantes la primera la elaboración de un plan estratégico que esperamos culminar en muy pocas semanas antes de finalizar el año en todo caso y que me comprometo a presentar en esta cámara

de acceder a él y de participar en él por cierto

participativa de irekia la segunda la relación de puestos de trabajo prevista desde la propia constitución de lanbide

la relación de puestos de trabajo va a ser el instrumento de gestión de la plantilla de lanbide un proceso complejo por las diferentes procedencias del personal pero necesario para su mejor funcionamiento y que vamos a abordar sin ninguna duda con garantías de éxito muchas gracias

honetan quisiera aprovechar la oportunidad sin entrar en excesivos detalles técnicos de lo que es un proceso de una enorme complejidad cuál es la confección de una relación de puestos de trabajo a la que profesionalmente me ha tocado dedicarme

de unos cuántos años en mi vida para explicarles cuál es a mi modo de ver la realidad de la propuesta que hemos realizado desde el gobierno

cuya competencia le corresponde a la viceconsejería de función pública verán que a mi modo de ver los datos

lo voy a dejar claro de entrada mire yo no quiero se vaya a la calle quiero dejarlo claro que nadie se vaya a la calle otra cosa es cómo deben jugar

los procedimientos para la cobertura de plazas dentro del gobierno la plantilla de lanbide es de quinientos setenta y cinco personas y así aparece en el presupuesto pero hay trabajando hasta novecientos en estos momentos estas personas contratadas laborales en muchos casos

y otras con la categoría de interinos de programa es decir sujetos a una temporalidad y no ocupando plaza presupuestaria se incorporaron para hacer frente sobre todo a las necesidades de tramitación

son personas que atienden por lo tanto un programa temporal un programa que en estos momentos y dada la situación de crisis demanda a nuestro modo de ver más personal que nunca en este contexto y sabiendo que si la situación económica mejora la necesidad de personal

si hay menos personas que atender puede haber menos personas para trabajar y de esa manera hemos intentado planificar lo que entendemos debe ser una estructural de la rgi nos parece que hacer una plantilla estructural

para determinar cuál debe ser la plantilla estructural no parece que es la actuación más responsable

tiene una responsabilidad pública por eso el resultado de nuestra reflexión nos ha llevado a entender que la plantilla estructural de lanbide

le recuerdo que en este momento de lo novecientos

como interinos de programa es decir ciento noventa temporales es decir en nuestra propuesta va a haber muchos menos temporales

pasaríamos de quinientos setenta y cinco a ochocientos catorce un avance cuestionable se me va el tiempo voy a avanzar qué ocurre con el resto hasta los novecientos crearíamos un programa con ochenta y seis personas como interinos de programa iríamos incrementando o descendiendo en función de cómo incrementen o desciendan dos variables y están escritas una los usuarios

y dos la tasa de desempleo en función del aumento o disminución de estas variables aumentaría o disminuiría esa bolsa de ochenta y seis nunca la de ochocientos catorce

en que nosotros hablamos de puestos de trabajo que se consolidan y de los que permanecen con su naturaleza temporal no estamos hablando de personas concretas yo no sé si las novecientos personas van a seguir trabajando en lanbide o van a tener que pasar a las bolsas del gobierno y nuevamente a ocupar una plaza

igual los procesos del gobierno ni siquiera la propia negociación con los sindicatos hace que pasen directamente de esa situación a la de ocupar una plaza de plantilla luego dejemos que jueguen los procesos establecidos de común acuerdo entre sindicatos y gobierno vasco la rpt

el acceso a los puestos de trabajo que se consolidan y puede que quizá no todas las personas que actualmente ocupan un puesto lo puedan hacer

se complica seguramente más luego en qué quedamos hay que hacerlo o no hay que hacerlo

hay condiciones salariales que cambian que cambian en función de cuál es la propia realidad del gobierno y eso tendrá que trabajarlo función pública
en cualquier caso como digo es una materia de función pública que desde lanbide intentaremos barkatu aburto jauna baino denbora amaitu zaizu

gracias señora presidenta buenos días a todos buenos días señor consejero

no décimos nada que no repitamos en esta cámara continuamente si nos referimos a la situación económica difícil que estamos vivienda y a su máxima expresión que es

que como usted dijo en el pleno monográfico de empleo es la principal preocupación de los vascos porque no vivimos como décimos

y los efectos de la crisis el desempleo los estamos sufriendo en primera persona las estadísticas arrojan

pero los representantes públicos debemos tener presente en todo momento ir más allá de esas cifras y de las estadísticas porque más allá se encuentran personas y familias que lo están pasando muy mal porque carecen de los recursos necesarios

a sus gastos cotidianos incluso su subsistencia los poderes públicos tenemos la obligación política y sobre todo la obligación moral de articular los mecanismos necesarios para ofrecer una respuesta satisfactoria a las necesidades que nos plantean los ciudadanos y cuando desde los poderes públicos no somos capaces de ofrecer estas respuestas estamos poniendo de manifiesto el fracaso de las políticas dirigidas como es su caso señor consejero a combatir y rebajar la cifras del desempleo

durante su campaña hicieron promesas dirigidas a rebajar las cifras del paro y en especial del paro juvenil que no nos olvidemos que uno de cada tres parados en este momento es menor de veinticinco años sin ir más lejos el entonces candidato a lehendakari el señor urkullu prometió

para los jóvenes en marzo de este año en una presentación muy solemne y aún más mediática el ya lehendakari arropado por usted mismo señor aburto y por la señora tapia presentaron públicamente su programa de reactivación del empleo dos mil trece dos mil dieciséis

y su dramática traslación al ámbito del empleo y entre sus objetivos todos ellos genéricos destacaban el de paliar la drástica destrucción de empleo el de ofrecer

y entre sus programas operativos destacaba el de facilitar la financiación para las pymes y autónomos

y el ochenta y cinco por ciento de los empleos con la creación de un fondo de seiscientos millónes de euros sobre este programa

anunciada de seiscientos millónes de euros y prometían una cantidad de trescientos millónes de euros aunque eso sí decían que cuando se agotase el gobierno vasco redoblaría sus esfuerzos

yo creo que seguimos sin encontrarla a través de este fondo se perseguía como decía y en palabras del propio lehendakari ofrecer oxígeno a mil ochocientos empresas y mantener diecinueve mil empleos porque para su gobierno señor consejero

empresa que no podrá volver a abrir y además

hasta aquí sus promesas y sus objetivos a conseguir en este ejercicio y es cierto que quedan aún pendientes los datos del último trimestre

anterior pero que lejos de invertir con su gobierno

y el pnv se lo han dicho más intervinientes aquí en esta mañana

gestor pero la verdad es que la realidad de los datos y las frías cifras pone a cada uno en su sitio

que les coloca a usted señor consejero y al señor lehendakari en un mal lugar ustedes durante un tiempo han presumido y han tratado de inocular el mensaje de que en euskadi se habían hecho las cosas mucho mejor que en el resto de españa

tan rudamente las cifras del desempleo además argumentaban que los datos ser incluso mejores sino fuera por el lastre que suponía la marca españa

su manta su mito se empieza a desmoronar y a desmontar y lo digo porque mientras que en el conjunto de españa las cifras comienzan a presentar una leve mejoría y digo leve porque hay que injustificados triunfalismos aquí en euskadi los datos apuntan a que lejos de conseguir sus objetivos en materia de empleo las expectativas generadas más mediáticas

y nuestra afirmación no responde a un planteamiento caprichoso sino que se basa en las cifras y no hay más que hacer un breve repaso de los datos de empleo en nuestra comunidad autónoma para corroborar

en el tercer trimestre del presente ejercicio la ocupación ha subido

si lo comparamos la evolución del paro en este trimestre con la del mismo periodo de los cinco años anteriores el descenso trimestral es mayor en ese periodo en la serie periódica del epa no se registraba un descenso del paro tan elevado en el tercer trimestre desde el año dos mil cinco desde septiembre del pasado ejercicio el paro

entre los menores de veinticinco años en los últimos doce meses el desempleo ha descendido

se encuentra a la cola junto con melilla en la tasa de variación trimestral de ocupación

han tenido incrementos del cinco coma dos y el cuatro coma ocho respectivamente en términos de descenso de la ocupación durante este tercer trimestre euskadi

y en lo referente al crecimiento del paro en el mes de octubre en comparación con el mismo mes del año anterior el país vasco

ha sido una cifra de casi el dieciocho por ciento solo superado por asturias

que es el de la tasa de actividad y en este la comunidad autónoma vasca tenemos una tasa de actividad siete puntos por debajo de la comunidad de madrid y doce por debajo de las islas baleares y en términos empresariales las cosas no es que vayan

mejor en julio y en agosto de este ejercicio cerraron sus puertas novecientos quince

que no vana a volver a abrir y entre enero y agosto se han perdido

han sido trescientos diecinueve empresas y en cuanto a los autónomos entre enero y agosto han desaparecido casi

actividades empresariales y a esto debemos añadir que las previsiones no son precisamente halagüeñas ustedes según su consejero de economía prevén perder para este ejercicio veinte mil empleos

la cosa no queda ahí ya que sus previsiones para el ejercicio que viene anticipan un incremento de paro de cuatro mil personas sin contar con el efecto fagor señor aburto los daños no engañan y yo me imagino que usted

a esa tan denostada reforma laboral y también a la marca españa

a los demás ustedes acaban de publicar como quien dice el decreto en el que se desarrolla el programa extraordinario de concesión de avales públicos para la financiación empresarial

el importe des de cien millónes de euros pero es que además

quien no llega a tiempo según el decreto no podrá recibir el oxígeno

sinceramente señor consejero creo que la gestión y los resultados obtenidos a través de la estrategia de reactivación desempleo son un reflejo de la gestión de este gobierno

ha desactivado la política de empleo del partido nacionalista vasco y de este gobierno no es más que un reflejo de lo que ha sido el gobierno en general caracterizado por la inoperancia por la falta de impulso y de liderazgo político

que se ha dedicado a deambular sin rumbo aparente desorientado y desnortado por la situación un gobierno resignado que realiza una política

a preguntar y dejaré lo demás para la réplica que medidas piensa acometer para hacer esa euskadi más atractiva a la que tanto nos hemos referido hoy aquí

que iniciativas pretende articular para que las empresas decidan invertir en euskadi y no se vayan a otras comunidades qué respuesta va a ofrecer para que los jóvenes

en busca de un futuro que aquí se les niega señor aburto qué va ha hacer en definitiva para que ese plan que presentaron tenga unos resultados sobre el papel pero

dicho con toda la humildad que se requiera pero qué estamos haciendo hoy toca uno

lo importante es darle al gobierno pase lo que pase

del mismo en el debate de investidura

estableció como prioridad del gobierno la defensa del empleo existente

para la generación de nuevos empleos sabiendo sin embargo de las limitaciones presupuestarias a las que nos enfrentábamos y también sabiendo señora llanos que el empleo no se crea por decreto solo le ha faltado en su intervención si quiere se lo apunto yo para la segunda

que hemos demorado la ley vasca de empleo al año dos mil quince

iría como un tiro yo creo que hay que ser lo más rigurosos posibles insisto en un tema que como usted dice

es la actividad económica y que desde el gobierno lo que se puede hacer

es colaborar para que esa actividad económica se pueda desarrollar en las mejores condiciones la actual crisis económica y la recuperación del empleo

de rigor presupuestario y la política de estímulo que incentive la actividad económica y coadyuve en la medida de lo posible en la generación de empleo

de una propuesta por el empleo con medidas concretas y realistas que tienen un impacto que queremos medir y cuantificar

sería muy difícil de evaluar pero en el plan aparecen datos concretos en cada una de las líneas de actuación y vamos a poder evaluarlas

la propuesta insisto se concretó en un documento sobre reactivación del empleo dos mil trece dos mil dieciséis un texto de trabajo abierto a aportaciones dicha propuesta fue remitida

con la búsqueda de consensos por ello a medida que se aplicaban las primeras medidas propuestas el gobierno ha ido implementándolas con las aportaciones provenientes de los acuerdos alcanzados con otras instituciones y otros agentes somos conscientes de que este plan es solo un primer paso y tiene un impacto a corto plazo y es paliativo no es un plan curativo para que las iniciativas que se contemplan tengan un alcance más extenso será preciso complementarlo

con una estrategia más amplia de reactivación económica que mejore la competitividad a medio plazo del conjunto del tejido

una estrategia que se sustente sobre cuatro pilares inversión pública industrialización innovación e internacionalización

apoyar y en definitiva a abonar el terreno pero no hay que olvidar que el empleo como decía no se crea por ley

en función de las expectativas y decisiones de carácter empresarial en este sentido es fundamental la colaboración entre las diversas instituciones

y en eso estamos señora llanos pero siendo esto necesario desgraciadamente como usted bien sabe no es suficiente la economía vasca está estrechamente ligada a la evolución del entorno económico estatal y del europeo

no son excesivamente halagüeñas aunque sí son ligeramente más optimistas que las de los meses anteriores en el último mes no ha habido decrecimiento económico aumenta la afiliación a la seguridad social y aumentan las exportaciones estamos sin embargo lejos de crear empleo de forma relevante

la demanda interna sigue siendo muy insuficiente es decir las tasas de desempleo solo empezarán a reducirse

suficiente el año dos mil catorce tampoco va a ser fácil lo anunció nuestro lehendakari vamos a vivir dos años muy difíciles

y dos mil catorce el pleno del parlamento vasco sobre el empleo celebrado el pasado ocho de marzo aprobó más de un centenar de propuestas de resolución en favor del empleo las propuestas aprobadas son heterogéneas y responden a muy diversos objetivos y áreas de actuación

más a medio plazo en términos de reactivación económica en todo caso tanto las intervenciones de los distintos portavoces como las propuestas de resolución contienen los siguientes principios como mínimo común denominador estamos en una situación de emergencia que exige

urgente de un plan de reactivación del empleo lo hicimos el mantenimiento y la generación de nuevos empleos debe constituir

es necesario facilitar la integración laboral de las personas más desfavorecidas para evitar que se cronifique

el empleo es un compromiso global para desarrollarlo son precisas la complementariedad y la colaboración entre todas las instituciones la cultura del diálogo y la concertación social deben contribuir al mantenimiento del empleo un plan de choque contra el empleo debe completarse con otras medidas de reactivación económica

el parlamento vasco apunta los siguientes objetivos que debe cumplir el plan de empleo favorecer el empleo y la inserción laboral de las personas más desfavorecidas especialmente los jóvenes

en aquellas obras y proyectos que tienen una incidencia directa en el empleo promover la cooperación institucional y la colaboración público privada por último se apuntan también los siguientes ejes de actuación como instrumentos comunes a las diversas propuestas del parlamento apoyo a la financiación de las pymes aprovechamiento de las capacidades endógenas de nuestros municipios y comarcas el emprendimiento y el autoempleo

formación para el empleo e inversión generadora de empleo el plan de empleo responde a nuestro modo de ver al mínimo común denominador planteado en el parlamento vasco

se pone en marcha con seis programas operativos fomento de pymes y desarrollo local fomento del emprendimiento fomento del empleo juvenil formación para el empleo empleo inclusivo

además el esfuerzo presupuestario del gobierno permitirá la movilización

en el ámbito de la financiación y de la inversión privada lo que supone que contaremos con un total de tres mil trescientos quince millónes de euros en el periodo dos mil trece dos mil dieciséis

van a tener un efecto positivo pero insisto no va a ser suficiente por sí solo para modificar el impacto en el empleo

las iniciativas contempladas en este plan ofrecerán una oportunidad de mejora laboral a un número significativo de personas persona también con cara y ojo señora llanos que van a poder beneficiarse de esa política

tendrán un carácter más paliativo al ser empleos temporales mientras que otras como aquellas relacionadas con la creación de nuevas empresas

en el tiempo por otra parte el acuerdo interinstitucional de revitalización económica y empleo suscrito por el gobierno vasco las tres diputaciones forales y eudel contempla un trabajo conjunto para diseñar y materializar

un fondo de solidaridad con el empleo y un fondo extraordinario vasco de emprendimiento

es voluntad del gobierno establecer convenios específicos para desarrollar aquellas iniciativas en las que la cooperación de varias administraciones

su mantenimiento y el aumento de la empleabilidad de una parte importante de la ciudadanía vasca el dos de julio se firmó también el acuerdo marco de colaboración para el desarrollo de un sistema vasco de emprendimiento que promueva y apoye de forma eficaz y eficiente el potencial emprendedor de la sociedad vasca este plan el plan vasco de emprendimiento se encuentra alineado con los compromisos y principios compartido

los partidos políticos pnv y partido socialista para conseguir una euskadi más moderna solidaria sostenible y competitiva muchas gracias eskerrik asko

mire tengo que reconocerle que me ha sorprendido porque usted y yo

ámbitos debatir mucho usted siempre ha tenido la costumbre de que cuando yo le solicitaba una comparecencia anunciaba un proyecto

la institución que usted dirigía para opacar totalmente lo que le veníamos a cuestionar

y no lo ha hecho y lo lamento porque probablemente se hubiera anunciado algo diferente algo distinto algo de choque

agradecido porque aquí se ha hablado hoy mucho esta mañana de mensajes buenistas

mensajes buenistas son los que usted ha realizado aquí hoy que no hacía más reiterar ya hemos oído en otras ocasiones el empleo es muy importante la situación es preocupante y hay que hacer algo hay que hacer de euskadi

son cosas que he ido sacando de declaraciones que han ido haciendo ustedes y los objetivos hoy aquí se ha hablado de una crisis sistémica es algo que suena muy apocalíptico los objetivos tiene que ser la creación de nuevas empresas el mantenimiento del empleo y el aumento de la competitividad de acuerdo pero es que usted está aquí el consejero está aquí y el gobierno está aquí para asegurar el cumplimiento de estos objetivos y nosotros consideramos

porque las cifras de desempleo son cada vez menor porque en el último octubre de los parados que se perdieron

de la población española sin embargo el número de parados representaba el veinte por ciento y eso es preocupante y lo que

de euskadi más atractiva cómo eso es lo que yo le vengo a preguntar

más atractiva qué medidas vamos a tomar para que sea más competitiva

usted decía en algunas intervenciones que al final del dos mil trece íbamos a ver

porque el resto de la sociedad usted habla de que

y unos números concretos que se van a mantener que se van a crear habrá que ver al final y ojalá se hubieran cumplido todos esos pero las cifras que tenemos todavía no nos ha dicho

cuál va a ser la evaluación de ese plan de reactivación las que tenemos en este momento son las que nos da la epa y las que nos da lanbide y esas

no son positivas en absoluto y usted cuando presentó el presupuesto perdón decía que

de ese plan para que consiguiese los objetivos vistas las cifras que tenemos

qué readecuaciones va hacer no sé si es que está esperando a la segunda intervención para anunciar esas medidas que yo le decía a las que estoy

hasta ahora de verdad ya nos gustaría porque eso significaría que la sociedad vasca va mucho mejor y que el empleo

se lo hemos dicho aquí hoy todos los grupos la gestión de

manifiestamente mejorable y lo que no se puede hacer es decir cuando se va tubacex a cantabria hay que ser más competitivo no hay que decir qué medidas vamos hacer para ser más competitivos y eso es lo que le pido qué medidas va utilizar para ser más atractivo porque en su presupuesto no hay ninguna novedad y yo lo que le solicito y lo que los vascos

es que el empleo lo ponga como una prioridad en la agenda política y en la agenda presupuestaria y eso va mucho más allá de unas declaraciones hoy aquí y de decirnos el plan de empleo que ya sabemos que no hay una barita mágica en esto

actuaciones y con documentos no se solucionan las cosas las cosas se solucionan con actuaciones y con propuestas y hasta ahora no las estamos viendo o las que

eskerrik asko mahaiburu andrea yo también le estimo mucho señora llanos

no traigo ningún plan estrella sería una irresponsabilidad

no podemos engañar a la ciudadanía si por algo se ha preocupado este gobierno

fiel con las noticias malas de los datos objetivos y con las noticias o los indicios

estar en el inicio lento de un proceso lento de una cierta mejora dicho con toda la prudencia que requiere el caso

pero sí le he dicho una cosa por cierto veo que ha estado muy atenta a todo el pleno porque de las cosas que ha dicho se ha estado refiriendo a nada de lo que yo he dicho ha estado atenta a los discursos del lehendakari de la señora tapia lo cual creo que es importante

las cosas que le he trasladado es insisto lo que estamos haciendo en el plan de empleo y sí le he dicho una cosa en pocas semanas además de hacer la evaluación que corresponda vamos a trasladar

con esos cuatro ejes que le he trasladado mire algunos datos porque a veces cuando

tan diversos como los que se dan con el empleo pues confundimos

usted se ha referido de manera especial a la población joven y se ha referido de manera especial a la epa mire datos del ine

para no engañarnos para el período octubre dos mil doce dos mil trece el descenso de personas jóvenes paradas en el estado fue del dos coma ocho por ciento mientras que en euskadi el descenso fue del once coma cuatro por ciento

de comparar lo que pasa en otros lugares porque a mí

para nada pero quienes estamos aquí debiéramos sentirnos

de que aquí las cosas vayan un poco mejor porque seguramente además que vayan un poco mejor es labor de todos y de todas quienes aquí estamos porque todos y todas desde las diversas instituciones seguramente estamos contribuyendo a que eso sea así y ese dato es un dato real

la población joven en euskadi un cuarenta y dos de paro la tasa de paro un cuarenta y dos coma dos por ciento dato dramático

y en españa un cincuenta y cuatro coma cuatro por ciento ahí están los datos y no vamos a seguir dando datos porque insisto

nos sirve únicamente para tener un cierto alivio y nada más

mire yo me voy a referir a un dato que creo que es positivo y creo que

dar o terminar dando algún dato positivo ya ha conseguido su objetivo de

que es que de esta cámara a la ciudadanía salgan algunos datos positivos que generen esa confianza de la que antes hablaba su compañero sémper para que la actividad económica funcione

debe decirse que no se trata de un aumento esperado

sino que es un verdadero cambio cuantitativo y cualitativo que

si continuara en los próximos meses estaríamos probablemente en un dato que indica que ese proceso lento empezarse a ver me conformo con trasladar ese mensaje positivo de cómo la afiliación a la seguridad social en el mes de octubre ha crecido

porque esas personas señora llanos también tienen cara

presidente andrea consejero en primer lugar he de decir que la orden que ustedes aprobaron en marzo de este año mantiene

modifica los límites patrimoniales de las personas beneficiarias

presentó eudel en la comisión interinstitucional para la inclusión social del dieciocho de febrero en lo que se refiere a los gastos de endeudamiento previo

estos conceptos en el total de las demandas presentadas en los municipios vascos supone un cincuenta y cinco por ciento ojo al dato señor consejero esto contrasta con el hecho de que la partida presupuestaria que se dispone este año para las aes

y que el gobierno vasco haya decidido unilateralmente no ampliarla porque según ellos

por tanto con la modificación de la orden con la situación actual de crisis económica con el aumento de las situaciones de pobreza y exclusión social y con aquella frase

han repetido en infinitas ocasiones que su prioridad son las personas y que las personas son el centro de sus políticas señor consejero usted sabe muy bien que el volcado de datos desde los ayuntamientos no se hace en todos igual esto implica que los datos facilitados a través de las preguntas y solicitudes de información formuladas por el grupo socialista

el grado de conocimiento de la realidad está limitado por tanto por ello entendemos que es necesario que ustedes contacten con cada ayuntamiento para saber cuáles son las demandas reales en torno a las ayudas de emergencia social para el año dos mil trece y en base a ellos hay que presupuestar las aes para el dos mil catorce por otro lado ante el argumento de que las aes no es un derecho subjetivo debo decir que la concesión de las mismas debe estar siempre basada en el diagnóstico

y paliativas de situaciones de exclusión social sobrevenidas por la escasez de recursos económicos garantizando que respondan siempre a las necesidades de las personas

es preciso por tanto que el gobierno vasco entienda que las modificaciones que incorpore este año la orden reguladora de las aes de veintisiete de marzo

y las nuevas situaciones de pobreza y exclusión social han derivado en un incremento de las solicitudes registradas en los ayuntamientos y que estos no pueden hacer frente a dichas demandas si no se produce

inmediata de hecho a día de hoy hay muchos ayuntamientos que han complementado a duras penas y haciendo un esfuerzo se lo garantizo

ya han agotado dicha partida consignada para tal fin o están a punto de hacerlo

que las cantidades que se han asignado a cada municipio en concepto de

insuficientes para atender a las solicitudes presentadas que los cambios

hace que un número mayor de personas puedan acceder a estas ayudas y en consecuencia se ha incrementado notablemente el gasto mientras que la cantidad transferida a los ayuntamientos desde el gobierno vasco por este concepto es idéntica a la del

eudel pide expresamente al gobierno que dote a los ayuntamientos de los fondos suficientes

los municipios se encontrarán en una situación de quebranto financiero que no han generado gestionando unas prestaciones económicas con las cantidades presupuestadas por otra administración

eudel no lo digo yo entenderá usted que son razones obvias las que hacen necesario apelar a la cordura y a la coherencia que debe tener el ejecutivo vasco

y que las situaciones de necesidad que se están dando en todos los municipios vascos están siendo

solicitando constantemente ayuda porque se están viendo desbordados por el incremento en el número de personas demandantes

señor consejero este parlamento habló el diez de octubre y llegó

y ahora estamos al arbitrio de la voluntad de su gobierno

que sepan reaccionar reaccionar a tiempo señor consejero el programa de su gobierno dice

el que da sentido a nuestro gobierno prestarán especial atención a los grupos más vulnerables sin permitir que nadie se quede atrás el compromiso del lehendakari y del gobierno vasco es con las personas

debo recordarle sus palabras en la comisión de empleo y políticas sociales en el mes de mayo decía usted literalmente las solicitudes de garantía de ingresos no están creciendo en estos momentos

este podría ser un dato por el cual podría ser que las ayudas de emergencia social tampoco tuvieran que crecer que se podrían comportar de manera similar a día de hoy

en el mes de octubre el número de perceptores de la rgi es

y decía también literalmente en esa misma comisión lo que sí sabemos

y este año señor consejero con las modificaciones que han incorporado ustedes a la orden y el no incremento

que nos facilitase ese dato por favor señor consejero en el mes de mayo decía también usted sobre lo que va a ocurrir con el desempleo con el empleo y con el posible efecto que eso pueda tener en los perceptores de la rgi pues tampoco tenemos datos en estos momentos

nosotros estamos haciendo un seguimiento semanal del paro registrado las cifras de mayo no son malas en este momento

pues yo le digo en el mes de octubre nuestra comunidad autónoma registra el mayor incremento de su vida interanual de parados ojo al dato señor consejero el total de empleados alcanza ciento setenta y ocho mil doscientos sesenta y siete el número de desempleados creció

respecto al mismo mes del dos mil doce un incremento del seis coma seis por ciento anual en la presentación de los presupuestos decía usted la partida de emergencia social no ha experimentado ningún crecimiento en tres años

eso lo ha omitido y es justo hacer un análisis real de la situación que vivimos es precisamente cuando se detecta la necesidad que se debe plantear con una dotación complementaria y entiendo que coyuntural para las ayudas de emergencia social

de octubre y ante los medios de comunicación mostró usted una firme voluntad de incrementar la partida de las aes de emergencia social así aparece registrada en algunos

en una resolución sobre la materia aprobada la semana pasada por el parlamento vasco lo cierto es que a día de hoy

ojo al dato señor consejero el ayuntamiento de donostia prevé

vitoria un millón cuatrocientos treinta y seis mil euros llodio ciento treinta y cinco mil barakaldo

sestao ciento ochenta mil irun ciento cincuenta mil eibar lejona doscientos ochenta y siete mil cuatrocientos basauri quinientos cuarenta mil euros ayuntamientos gobernados por distintos partidos

estos son solo algunos ejemplos que he cogido pero hay muchos más todos los datos que yo le proporciono

un porcentaje que se traduce en un veinticinco por ciento más de demandantes de las aes ojo al dato señor consejero datos

por lo tanto razones haberlas las hay para interpelarle señor consejero para saber si de verdad es su voluntad la voluntad de su gobierno de cumplir con el mandato

sobre las ayudas de emergencia social besterik gabe mila esker eskerrik asko

su interpelación señor sarasua a un viejo programa de radio que

solíamos escuchar pero la verdad es que no voy a referirme a ello porque creo que el tema es enormemente

creo que no voy a sorprender a nadie si reitero el mensaje que desde este verano venimos repitiendo en relación a esta materia a fecha de hoy a fecha de hoy no disponemos de remanentes que nos permitan destinar a los ayuntamientos de euskadi unas partidas

a todas las demandas que están recibiendo y que en muchos casos en muchos casos están solucionando con aportaciones de los propios ayuntamientos sirva la ocasión también

el gesto solidario que realizan con sus ciudadanos y ciudadanas hay otros ayuntamientos que bien por una menor demanda o por una mayor contención en la aplicación de las partidas no han agotado sus recursos esta situación no es nueva

se viene repitiendo cada año en muchos ayuntamientos y me sorprende de verdad que esta interpelación venga del grupo socialista insisto me sorprende de verdad en cualquier caso

no voy a perder la esperanza de poder articular alguna partida

y atender todas las demandas habidas le aseguro que estamos empeñados en la medida

articular recursos esta es una prioridad y le voy a trasladar más señora sarasua porque me gusta ser transparente

una gran frustración de este consejero que le habla pero no es por falta de voluntad no es por falta de voluntad de hecho tal y como explicamos en la presentación de nuestros presupuestos

un notable incremento exactamente del dieciocho coma cinco por ciento

a ayudas de emergencia social y ese incremento del dieciocho coma cinco por ciento

lo hacemos cuando usted bien sabe que todavía disponemos de seiscientos millónes menos que en el dos mil doce e

no ya del dos mil doce sino también del dos mil once hasta los veinte millónes quinientos mil señora sarasua esto es algo que

pero no voy a pretender eso dicho esto quiero recordar cuál es el marco legal en el que nos movemos y hasta dónde alcanza la responsabilidad del gobierno vasco con la ley en la mano

esté quien esté al frente de él el decreto cuatro barra dos mil once

la naturaleza subvencional de dichas ayudas naturaleza subvencional y su sujeción a la existencia de crédito consignado para esa finalidad

forman parte del sistema vasco de garantía de ingresos e inclusión social al igual que la renta de garantía de ingresos y la prestación complementaria de vivienda los recursos excedentarios de los que podamos disponer señora sarasua

aquello que es derecho subjetivo como usted bien sabe y es a complementar la renta de garantía de ingresos para que todas y cada una de esas

puedan cobrar su renta de garantía de ingresos sabe señora sarasua cuál es la renta de garantía de ingresos

por ejemplo de la generalitat de cataluña pues algo por encima de los sesenta millónes de euros sabe señora sarasua que del total

se dedican a rentas de garantías de ingresos del total de los recursos del estado saben cuántos se destinan en euskadi el treinta y ocho coma seis por ciento le digo el dato simplemente para que en la medida de lo posible todos y todas orgullosos del sistema de protección social que hemos generado y sí hay que mejorarlo y hay que mejorarlo a través de la mejora de las ayudas de emergencia social pero partiendo de la realidad que tenemos insisto

cuyo objetivo es regular el sistema de garantía de ingresos e inclusión social

entre lo que es una subvención un carácter subvencional y lo que es un derecho subjetivo

y mantuvo las aes como sujetas

de cada momento el hecho de que el propio artículo dos del decreto cuatro barra dos mil once añada que el gobierno vasco y los ayuntamientos en su calidad de administraciones públicas competentes consignarán con carácter anual las cantidades

no implica eso de cantidades suficientes no implica la suposición de que los presupuestos puedan incrementarse en cualquier momento o situación como usted bien sabe en el dos mil once y en el dos mil doce tampoco hubo incremento alguno

y la situación de los ayuntamientos también era de necesidad señora sarasua

con el fin de que las entidades implicadas hagan las previsiones precisas a la hora de elaborar sus presupuestos sin embargo tambiénsupone que no siempre será posible

recibidas la cuantía aplicable en cada caso particular dice el decreto establecida según el procedimiento previsto en el artículo anterior deberá en cambio insisto en este dato señora sarasua deberá en cambio ser

por cada ayuntamiento competente teniendo en cuenta las disponibilidades presupuestarias existentes es decir la aplicación de esas cantidades las debe realizar cada ayuntamiento que no escuchemos como hemos tenido ocasión de escuchar a algún alcalde

en el momento en que los recursos que se ponen encima de la mesa son los municipales dijo ahora sí a partir de ahora controlaremos las cantidades que no tengamos que volver a oír eso conviene señalar

es decir no establece un carácter optativo sino que establece una obligación de las entidades gestoras en este caso de los ayuntamientos otra cuestión es que cada entidad analice las circunstancias que le atañen y decida hacer minoraciones o no

por tanto cuando a pesar de prever que la asignación será insuficiente algunas entidades deciden abonar los máximos a conceder pero no voy a extenderme en este apartado porque insisto vaya por delante mi agradecimiento a aquellos ayuntamientos y no el mío

de esos municipios que se van a poder beneficiar de más ayudas al principio de este ejercicio se preveía que podría haber problemas de este tipo sobre todo porque

del ararteko y también de eudel como usted ha reconocido se modificó la orden

ello implicaba un incremento tanto en las posibles personas beneficiarias como en las cuantías pero era cumplir la ley no teníamos otra alternativa era cumplir la ley cumplir sobre todo con el principio de legalidad con el principio de jerarquía normativa teniendo en cuenta tal circunstancia

hizo llegar a todas las personas responsables de los servicios sociales de base

relativo a las previsiones y minoraciones que las entidades gestoras debían realizar en todo caso hay demasiadas diferencias en la situación actual de las entidades

entre las entidades que han realizado minoraciones algunas no tendrán suficiente y otras puede que sí lo mismo ocurre entre las que no han minorado

ya están utilizando como hemos anticipado presupuesto propio todo esto hay que analizar y hay que analizar sobre todos los criterios y lo estamos haciendo señora sarasua todo lo anterior vuelve a poner de manifiesto la necesidad de una revisión de los criterios de distribución

en la comparecencia del pasado veinte de mayo en cuanto al próximo ejercicio insisto veinte coma cinco millónes de euros un dieciocho coma cinco más destinado a las ayudas de emergencia social ello no implica

plantearse la necesidad de gestionar el presupuesto con rigor y tampoco que las cantidades previstas sean de por sí solas suficientes para poder atender
a una demanda que en este momento no sabemos cuál va a ser eskerrik asko aburto jauna

noches de insomnio pasan muchas familias que están pasando dificultades

efectivamente esto es una cosa muy seria señor consejero yo le agradezco que tenga esperanza pero le agradecería mucho más que tuviera voluntad y que su gobierno tuviera voluntad para ampliar

en este momento en un momento coyuntural de dificultades y donde yo los datos que le he dado lo avalan

que todas esas familias recibiesen esas ayudas sociales sin ningún problema por qué podría venir del grupo socialista y de quién no iba a venir si el grupo socialista

política en este parlamento por y para los ciudadanos está claro que nosotros

los socialistas han estado en el gobierno pero tampoco que ustedes nos tengan nada que reprochar en el dos mil nueve y en el dos mil diez se ampliaron

y la situación que yo le he dado en el dos mil trece se presenta bastante peor por lo tanto sus propios argumentos

y dejar claro es que lo que nosotros pedimos es muy coherente y que son los datos los que hablan no es que habla el partido socialista es que hablan los datos es que hablan las encuestas

señor consejero es que los datos son los que están hablando por lo tanto nosotros estamos haciendo uso de este parlamento para ver si conseguimos

nosotros hemos hecho esta interpelación precisamente para saber si van ha hacer un cumplimiento de ese acuerdo que se dio en este parlamento como en la ocasión en la que gobernaban los socialistas los acuerdos que se daban en este parlamento dieron pie a que se amplíen a esa partida presupuestaria

primero que se amplíe la dotación presupuestaria destinada a financiar las ayudas de emergencia social consignando la cantidad suficiente para garantizar que los ayuntamientos puedan dar respuesta a las solicitudes

dieciocho barra dos mil ocho para la garantía de ingresos y para la inclusión social y de acuerdo a la orden de veintisiete de marzo de dos mil trece que ustedes modificaron para dar entrada a más perceptores pero que sin embargo no dotaron con más recursos

que el gobierno vasco tiene y debe dar la máxima prioridad a la tramitación de las oportunas

las ayudas de emergencia social en los ayuntamientos también en tercer lugar que el proyecto de presupuestos del dos mil catorce consigne la partida económica

que cumplen con los requisitos establecidos para tal fin yo le he proporcionado unos datos y unas estimaciones y usted

qué situación es la que estamos viviendo en este momento la comunidad autónoma vasca si las personas que van a pedir ayudas es porque lo necesitan y evidentemente los datos

ha incrementado un cinco por ciento si la tasa de paro interanual se ha incrementado un seis por ciento pues lógico que las aes también se incrementen porque bueno

subjetivo las ayudas de emergencia social son precisamente de emergencia y cubren gastos de alquileres intereses de créditos

la situación del desempleo no mejora en euskadi ya le he dicho los datos así se desprende de los últimos resultados conocidos en el mes de octubre se lo he dicho ciento setenta y ocho mil doscientos sesenta y siete desempleados

anterior un seis coma seis por ciento por lo tanto señor consejero si yo solo le estoy pidiendo que incremente la partida que necesitan las personas las personas que están pasando

que peor lo están pasando las personas que están sufriendo los efectos de la crisis razones haberlas las hay y usted lo sabe señor consejero por lo tanto le pido por favor que tengan voluntad que su gobierno tenga voluntad y desde luego que me responda si van a cumplir

yo creo que si se pudiera habría que incrementar las ayudas de emergencia social lo mismo que estoy convencido que a usted le hubiera gustado que

se hubieran incrementado estoy convencido de que le hubiera gustado que se hubieran incrementado no pudo ser entonces y ahora yo no sé si va a poder ser le he sido franco desde el primer momento

que a día de hoy no es posible y se lo digo créame desde la frustración

hemos cumplido hasta el momento todas y cada una de las proposiciones no de ley que han afectado a nuestro departamento que han sido aprobadas en esta cámara

insisto existe voluntad de este consejero en la medida de lo posible por cumplir con esa proposición no de ley pero a día de hoy

que a día de hoy no es posible entre otras cosas señora sarasua porque tenemos que cumplir con un derecho subjetivo con una obligación no de una proposición no de ley sino con una obligación de ley con la ley de garantía de ingresos que dice que esas sesenta y dos familias

tienen que percibir su renta de garantía de ingresos y eso es prioritario y eso es a lo que vamos a dar contenido económico y lo que no vamos a hacer

es utilizar dinero de políticas activas de empleo para dotar de más cantidad a la renta de garantía de ingresos

de otras partidas de otras partidas que no afecten a políticas activas de empleo por lo tanto yo no sé si voy a poder cumplir lo voy a seguir intentando no lo sé pero en todo caso ha quedado demostrada nuestra voluntad para el año dos mil catorce de incrementar esa partida

desde los diecisiete millónes trescientos mil hasta los veinte coma cinco millónes

insisto con seiscientos millónes de euros menos todavía que en el año dos mil doce un incremento en las ayudas de emergencia social del dieciocho coma cinco por ciento eso es algo que está encima de la mesa en estos momentos que se apruebe o no se apruebe esa partida no depende solamente

ni del equipo de gobierno por lo tanto una partida que va a ser necesaria sin ninguna duda

a día de hoy no lo sabemos ni usted ni yo y lo que no sabemos a día de hoy es qué va a ocurrir el año que viene con esas con todas y cada una de esas familias

necesidades reales porque la ayuda de emergencia social

entre otras cosas que esto no nos gusta decirlo a veces muy alto se incrementa

esos cambios de criterio a parte de por eso se incrementa también por los cambios normativos que se dieron en otro tipo de prestaciones y que hace

acceder a las ayudas de emergencia social si tuvieran renta de garantía de ingresos no accederían a las ayudas de emergencia social y sin embargo ahora no les queda otro remedio

en todo caso nosotros también hacemos políticas para la ciudadanía insisto en el dato es un dato además que no es

del que todos nos debiéramos sentir orgullosos el treinta y ocho coma seis por ciento de las rentas de garantías que se pagan en el estado se pagan aquí con cargo a los presupuestos que en este parlamento se aprueban y ese es un dato que tenemos que tener como referencia

que esas sesenta y dos familias todos los meses puedan cobrar esa renta de subsistencia que hace

su dignidad se mantenga intacta o se mantenga lo más visible

gracias presidenta buenos días señor consejero evidentemente

la respuesta será idéntica nosotros efectivamente queríamos saber si este gobierno va a cumplir el mandato parlamentario del día

le preguntábamos cómo va a cumplirlo y si va a cumplirlo y evidentemente usted ya ha respondido más bien que no o que no sabe o que parece que no será posible aunque efectivamente no pierde en todo caso

nosotros ya lo denunciamos durante el no debate

que con toda seguridad le dijimos al consejero de hacienda le dijimos al propio gobierno que con toda seguridad esa cantidad iba a ser insuficiente y propusimos aumentarla por lo que ahora debemos insistir en la misma idea fue una de nuestras reivindicaciones

a las ayudas de emergencia social posteriormente ha habido incluso un acuerdo parlamentario una proposición no de ley un mandato de obligado cumplimiento y por lo tanto la pregunta es evidente si el gobierno va a cumplir esa iniciativa aunque ya digo que usted ya ha respondido que no aunque no pierde en todo caso la esperanza nosotros no podemos olvidar que son cuantías

para la parte más débil de la sociedad y la cuestión no es que se deja tirados a los ayuntamientos o que claramente se les perjudica que obviamente también la cuestión es sobre todo que se deja tirados a muchos ciudadanos

lo que nos preocupa no me compare por favor la situación de euskadi con la situación de otras comunidades autónomas evidentemente estamos mejor aunque también es cierto por otro lado que cada vez estamos digamos menos mejor que otras comunidades autónomas en todo caso nuestra obligación es

al gobierno de aquí que cumpla los mandatos parlamentarios y sobre todo que destine el dinero de los ciudadanos y los recursos públicos disponibles a lo realmente y que si hay recursos públicos disponibles que evidentemente son escasos nuestra obligación también es recordarle al gobierno que el gobierno algo debería poder hacer

tan escasos de otro modo en fin entenderíamos que la afirmación permanente suya de que no hay dinero es una simple excusa
esa es la pregunta que nosotros le planteamos eskerrik asko maneiro jauna erantzuteko

sí con rotundidad pero ya he trasladado en la interpelación anterior que hoy no es posible

y también le reitero que para mí es una frustración importante no poder atender

a esa demanda dos veces he sido interpelado

por ayuntamientos parlamentarios y también por medios de comunicación y la respuesta sigue siendo la misma no disponemos en estos momentos como he dicho antes

y dar cumplimiento no solo al mandato parlamentario que en sí mismo es importante sino señor maneiro a nuestro propio deseo

presidenta evidentemente la misma respuesta si no habilitan las cantidades necesarias no será por falta de voluntad política por falta de qué entonces

y por qué no hay dinero suficiente porque no se han impulsado las reformas que euskadi necesita en los últimos tiempos

el partido nacionalista vasco por qué ustedes boicotearon la reforma fiscal que era tan indispensable por qué han llegado a una reforma fiscal que es insuficiente por qué no han luchado más y antes contra el fraude fiscal

más recursos si lo que el gobierno viene a decir durante todos los plenos de control es que no hay dinero pues da la sensación de que el gobierno es un simple administrador

que pueda impulsar e impulse las reformas que euskadi necesita y no se ha hecho

ni reforma del sector público societario ni una reforma fiscal antes y mejor que la actual ni una lucha mayor y anterior contra el fraude fiscal esto es lo que no se ha hecho y como no se ha hecho tenemos ahora estos problemas

lehendakari sailburuok legebiltzarkideok meros administradores de recursos públicos señor maneiro no no señor maneiro

menos de euros que en el dos mil doce

la misma cantidad para ayudas de emergencia social la misma cantidad

esa es una decisión política para mí es una decisión política y de calado que quiere decir además que las personas

y lo demás está dicho créame que de haber tenido la disponibilidad económica no estaría pasando por este mal trago

hasta dos veces en el día de hoy con el mismo tema no obstante le reitero la partida para el próximo año

importante y cuando pongo datos de otros lugares señor maneiro lo hago simplemente para que sepamos dónde estamos para que sepamos analizar la realidad que tenemos en su justos términos por lo menos yo intento de esa manera insisto un aumento notable y para este año seguimos intentando en la medida de lo posible dar solución a las demandas de los ayuntamientos mire es necesario realizar un análisis

sobre los criterios de distribución de las ayudas de emergencia social y lo vamos a intentar hacer dicho esto quiero recordar una vez más

los ayuntamientos las instituciones locales no son meros intermediarios tienen una capacidad de gestión con las ayudas de emergencia social por qué

y no son suficientes en barakaldo por qué por qué porque hay diferentes posibilidades de gestión

de estudiar porque tienen ese deberá que les obliga desde el gobierno miramos

viendo a dónde no hemos llegado y miramos el futuro viendo que vamos a llegar allí donde hasta ahora no habíamos sido capaces muchas gracias eskerrik asko

usted hace unos días formó parte de la reunión del consejo vasco de finanzas una reunión a nuestro juicio

muy importante porque se trataba de determinar cuáles iban a ser las aportaciones de

el reparto de ingresos del conjunto de las instituciones del país vasco y esa reunión tuvo a nuestro juicio dos actos un acto que fue el formal en el que daba la impresión de que se habían resuelto los temas que en ella se tenían que sustanciar y un acto público posterior al final

que a nuestro modo de ver resultó un acto

para la situación económica para la credibilidad institucional para la fiabilidad en los objetivos

es decir que en un momento en el que es necesario que haya claridad que haya concreción que haya buen gobierno que haya transparencia en los actos políticos lo que se tradujo de esa reunión del consejo vasco de finanzas es que

se habían hecho mal los sistemas de medición para determinar esos datos

para llegar a esas aportaciones era una utilización que estaba o que estaba trampeada que además se maltrata a unos territorios en beneficio de otros que determinadas decisiones

afecta gravemente sin poder ser corregida a otros territorios en fin un espectáculo que si hubiera que resumirlo de alguna forma

esa previsión de recaudación de ingresos y ese sistema de aportaciones que se plantea de esa reunión del consejo vasco de finanzas es fiable o no es fiable es de verdad

instituciones que tienen que colaborar y que tienen que compartir y que van a declararse la guerra

ponen encima de la mesa los datos de verdad o se guardan alguna carta

de cuáles van a ser las previsiones de recaudación por lo tanto de en función de las previsiones de recaudación cómo se van a efectuar los gastos

en un momento en el que desde la responsabilidad

se están haciendo trabajos extraordinarios para poder compartir para poder sumar para poder dar gobernabilidad a las instituciones no es de recibo que desde fuera del gobierno se esté planteando que hay que sumar para que euskadi funcione para que avance

para que se puedan sostener los servicios públicos para que se puedan hacer las políticas sociales y que quienes tienen una misión un papel determinante en todo ese

se acusen los unos a los otros de que se trabaja con cartas trucadas

sensación de muchos entre otros de nuestro grupo entre otros de este interpelante

los datos que se plantean para confeccionar las previsiones de recaudación

espero incluso que comparta esa preocupación y por eso le quiero pedir como parte de ese consejo vasco de finanzas no precisamente además como una parte que a mi modo de ver montó el lío pero sí como una parte que estaba allí y que vio el lío y que incluso tuvo que intervenir en el lío que nos dé claridad

que nos dé seguridad que nos diga que efectivamente hay una colaboración interinstitucional que efectivamente la previsión de recursos es eso que no hay trampas que no hay cartas trucadas necesitamos esas respuestas por eso le interpelamos y yo espero que usted que tiene la obligación la necesidad de dar

esa transparencia a algo tan importante como es la confección de los ingresos presupuestarios pueda

y en el caso de que no fuera así seguiré insistiendo porque creo que la ciudadanía

a la que le hemos pedido una responsabilidad añadida un esfuerzo añadido con una propuesta de reforma fiscal

y que va a hacer ese esfuerzo fiscal tiene que saber que sus instituciones juegan con todas las cartas encima de la mesa juegan con limpieza suman esfuerzos ponen todos los recursos encima de la mesa porque esos recursos se necesitan en políticas públicas y en políticas sociales

a su interpelación tengo que responder y en el consejo vasco de finanzas

que se aprobaron por unanimidad fue el cálculo de los recursos tributarios derivados

provenientes de la recuperación de ayudas fiscales de años anteriores en ejecución de la doctrina jurisprudencial comunitaria hubo que recortar treinta y dos coma nueve millónes de euros unanimidad

era cuál es la previsión de recaudación para el año dos mil trece

once mil ochocientos setenta y cinco millónes unanimidad en las cuatro instituciones

tercer acuerdo cuál es la previsión de recaudación para el ejercicio dos mil catorce

del consejo vasco de finanzas cuarta materia sujeta a debate cuáles son los coeficientes

se tienen que abonar por las instituciones forales a las instituciones comunes unanimidad entre las cuatro instituciones

con eso ya llevo cuatro acuerdos donde hay unanimidad y con eso qué le quiero decir que las cuatro instituciones en estas cuatro primeras materias

qué es reflejo de ello lo que resulta de ello resulta

trabajada entre las cuatro instituciones ese día se aprueba

hay muchas reuniones entre las cuatro instituciones tenemos la misma

de la realidad económica y hay un acuerdo segundo respecto al pasado cómo ejecutamos

y cómo los distribuimos también tercero

indicadores evolución de la economía cómo va a crecer el pib

un acuerdo sobre la previsión de recaudación del catorce y el cuarto gran acuerdo es por eso yo

cómo aporta cada territorio para el año dos mil catorce a la financiación de las instituciones comunes con los coeficientes horizontales

por unanimidad entre las cuatro instituciones

vamos a continuar quinta materia tratada en el consejo vasco de finanzas

el fondo general de ajuste que tiene unas características a efectos de hacer una distribución interna

se acuerda la participación del gobierno y de las diputaciones de conformidad el gobierno con su coeficiente vertical y las diputaciones redistribuyendo su vertical a su vez

unanimidad instituciones que pueden resultar beneficiarias del fondo general de ajuste gipuzkoa unanimidad bien eso es

análisis de cuáles tienen que ser las directrices de política económica para el dos mil catorce

instituciones esa es la realidad muchas veces luego el juego político el discurso político permite en el ejercicio de la libertad de expresión planteamientos que pueda haber distintos plasmarlos

pero yo le estoy relatando como

cómo se tomaron ese conjunto de acuerdos todos por unanimidad las previsiones de recaudación del año dos mil trece la preliquidación de los recursos tributarios derivados de las ayudas fiscales a recuperar los coeficientes yo creo que ustedes en una intervención iba por ahí los coeficientes que hay

nada señor prieto yo se lo aclaro y creo que con esto lo dejo claro ante la opinión pública nadie discute esa cuestión allí de hecho se aprueba por unanimidad si no

se hubiera tachado de que es una distribución injusta injustificada desproporcionada infundamentada no soportada nadie discute eso las cuatro instituciones están de acuerdo luego

igual que yo los dirigentes pueden hacer también desideratus políticos

hay determinadas cuestiones que les gustarían que se regularan o que fueran de otra manera

uno puede hacer manifestaciones pero yo le estoy trasladando en el órgano institucional interinstitucional qué es lo que se ha acordado

de conformidad con el nivel o el grado de responsabilidad institucional que por razón de la posición que ocupa

a lo que me corresponde a mí que es darle cuenta a usted y a la cámara

y paso a exponerle también otra cuestión que es la séptima que hay una materia de asuntos varios donde se plantean dos cuestiones

a unos criterios en materia de actualización de balances

de recursos tributarios derivado del impuesto de sociedades que planteó

aplicación por el modelo de reparto ordinario o hacer una excepción con un acuerdo

como nuestra legislación financiera en la materia establece que hay que esperar a la finalización del ejercicio para hacer la evaluación de cómo ha ido el año

acuerdan que la petición del diputado general de gipuzkoa que está

se debatirán en el siguiente consejo vasco de finanzas y hubo un asunto más también

que planteó el diputado general de álava que era el relativo a que tenemos que empezar

para actualizar y aprobar una nueva ley de metodología y de aportaciones de las instituciones forales a las instituciones comunes

diputado general de álava sobre ese tema también unanimidad

un grupo de trabajo conformado por dos representantes de las cuatro instituciones para que vaya trabajando en la materia relativa a la renovación y a la puesta en marcha de una nueva ley de metodología y aportaciones a sostenimiento

bien eso es el relato real de lo que pasó

en fin cada uno tiene que ejercer su diferencia política o como entienda oportuno yo creo que si hay algunas cuestiones que se consideren que haya que modificar en nuestra relación institucional

advierto lo siguiente los vascos aportamos al sostenimiento de las cargas de este parlamento y de nuestras grande políticas la ertzaintza

en base a la renta los vascos aportamos al sostenimiento de las cargas comunes del estado en base a la renta

que se entienda que es mejor y que es más solidario

qué hay más solidario que aportar en función a la renta de cada territorio

de poderes territoriales distribuidos no suelen ser los más justos no sea que luego termine

estén por población aportando menos de lo que tienen que les corresponde por territorio

de la utilización del criterio de la renta los territorios aportan en función de la renta

determinan qué parámetros qué indicadores estructuran

desde el lado de la renta además desde el lado de la demanda y de la oferta el de la renta está perfectamente estructurado por tanto vamos a trabajar pero yo creo que

es solidario y sobre todo aportar en función de renta yo creo que es un sistema muy sustentado muy asimilado